buenos días

es incuestionable como factor de desarrollo y bienestar en una sociedad moderna y avanzada como la vasca

son conocidos por todos ustedes los beneficios que la práctica deportiva tiene en la salud de las personas sin embargo en la medida en que el deporte en todas sus modalidades ha ido evolucionando ha cambiado la forma de entender la práctica deportiva alcanzando un mayor protagonismo la actividad física y el desarrollo del bienestar de la persona a nivel integral

en este ámbito en los últimos años se han venido implementando diversos programas con el objetivo de promover la actividad física y combatir la inactividad y el sedentarismo brindando al efecto servicios de orientación y acompañamiento por ello es necesario que todos los programas de promoción de la actividad física

este es el objetivo que persigue la proposición de ley que presentamos hoy en la cámara saben ustedes que en la anterior legislatura estuvimos prácticamente a punto de

y las comparecencias se habían producido este hecho va en sintonía con las necesidades detectadas en el plan vasco del deporte en el cual ya se advirtió de la necesidad de regular los sectores profesionales del ámbito de esta ley

y situaciones de infracualificación en cuanto al contenido del proyecto me gustaría recalcar la importancia de abordar el tema del deporte con una perspectiva transversal

a las personas consumidoras al medio natural al uso del euskera y a otros aspectos como el ocio o la inserción social necesitamos dotarnos de un marco

bajo la dirección o la supervisión de personas sin la formación necesaria

el acceso al ejercicio de las profesiones no se limita a la posesión de un título de educación superior sino que también se permite la acreditación de cualificaciones mediante títulos académicos de diferentes niveles y certificados de profesionalidad de carácter oficial la ley no se circunscribe solo al ámbito de la competición o el deporte federado el texto es fiel a lo expuesto por la carta europea del deporte del noventa y dos respecto al deporte y a la actividad física englobando

tiene por objeto la expresión o mejora de la condición física o psíquica y el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles

promoviendo entre otras cosas la realización de políticas para la igualdad de trato de oportunidades en el acceso a las

y por último me gustaría destacar que la iniciativa presentada recoge básicamente el texto articulado de una anterior iniciativa que se trabajó y negoció ya con otros grupos

en su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de grupos parlamentarios además de todos los colectivos y agentes afectados con los que hemos podido reunirnos y recibir

insistir y resaltar el amplio consenso alcanzado en la ponencia de la legislatura pasada y hacer un llamamiento a que logremos este mismo consenso como parece que así va a ser

alertan de la mala situación laboral de cualificación por la que pasa el sector del deporte

el sesenta y uno por ciento no tiene formación o titulación adecuada para desempeñar las tareas que desarrolla de ellas

sin embargo de ese sesenta y uno por ciento más de la mitad sí tiene experiencia equivalente a más de setecientos cincuenta horas

profesionalización hay que añadir que más de la mitad de las actividades desarrolladas se da por personas voluntarias

además del abuso que puede haber del voluntariado a quien hay que agradecer su labor por supuesto pero

puede crear el efecto contrario y resultar perjudicial para la salud los datos también arrojan otra realidad preocupante y es que además de tratar de un sector infracualificado paradójicamente

no pueden encontrar una salida profesional adecuada por todo ello consideramos urgente atajar esta situación y hemos presentado esta proposición de ley que no es nueva en este parlamento

que vendrá acreditada oficialmente por un título de formación por un certificado de competencia o por una experiencia profesional formalmente reconocida o bien por el concurso de más de una de las tales circunstancias es decir las cualificaciones se podrán llevar a cabo de dos maneras a través de la formación para el ejercicio adecuado de sus actividades deportivas

que en la actualidad ejercen en el deporte y que sin embargo carecen de una certificación oficial que les habilite para ello esta cualificación

profesional y a quienes lo hagan desde el voluntariado los y las profesionales deberán estar inscritos en un registro administrativo de profesionales

de la actividad física y del deporte de carácter público y accesible

herritarrek nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko duten eskubidearen bermea bultzatzen du para que las personas tengan tiempo suficiente para adaptarse

y fijamos el máximo en el año dos mil veinticinco y estamos convencidos y convencidas de que así se logrará el equilibrio entre quienes ya ejercen y quienes se deberán de incorporar somos conscientes de que la ley por sí sola no solucionará de un día para otro los problemas existentes

y establece un orden desde el que comenzar con los cambios que habrá que ir implementando en muchos casos con la adopción de otra serie de medidas complementarias así en la aplicación progresiva de la ley

la falta de profesionales con las cualificaciones previstas en la ley gure taldetik uste dugu

eta noski kirola hezitzaileagoa eta sozialagoa lortuko dugu a pesar de que se trata de una ley corta quienes la hemos trabajado anteriormente conocemos de su complejidad por ser muy técnica y por referirse al entramado deportivo pero también al sistema educativo llegó a este parlamento por primera vez en dos mil dieciséis y volvió en dos mil diecisiete ambas de la mano del gobierno vasco durante la pasada legislatura llegamos a trabajar hasta dos textos diferentes en la ponencia

pero no consideramos que haya sido tiempo perdido todo lo contrario ha sido tiempo que nos ha permitido intercambiar

y también incorporarlas y matizarlas a la proposición que hoy presentamos y que tomamos como referencia del texto que en dos mil diecisiete ya trajo el gobierno de urkullu obviamente es a partir de ahora cuando tenemos que trabajar entre todos y todas

desde luego esa es la disposición de los grupos que sustentamos al gobierno besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko molina andrea eh bildu taldearen ordezkaria

bueno decir que desde el grupo vox lejos de enfrentamientos políticos y analizando el proyecto de ley presentado y viendo si es bueno

obviando además quien se ponga las medallas al mérito es decir solo valorando si es bueno o no para todos los ciudadanos hemos decidido que es bueno

tanto para el bienestar físico y psicológico de las personas por ello creemos que también los profesionales que imparten las diferentes especialidades deportivas deben estar lo suficientemente cualificados para velar por la salud y el perfecto desarrollo físico de las personas a las que imparten estas clases

y supervisión de profesionales cualificados puede conllevar riesgos importantes que generarían un efecto negativo en el desarrollo y beneficio de dichas actividades deportivas

gracias presidenta egun on buenos días lehendakari consejera consejeros señorías bien en este turno de explicación de voto en relación con esta proposición de ley pues queremos manifestar que para nosotros para el grupo popular ciudadanos es una regular las profesiones las actividades profesionales que se mueven alrededor de la actividad física y el deporte está claro que es necesario

de profesiones deportivas como lo tienen otras muchas comunidades autónomas y despejar algunas dudas sobre el ejercicio de estas profesiones que son tan importantes y están tan en contacto con deportistas de todas las edades de todos los niveles

un correcto modo de práctica deportiva o de práctica de la actividad física cuando se ejerce

es una casuística muy variada desde luego en la anterior legislatura realizamos un trabajo

muchas de las personas que hoy estamos aquí que seguiremos realizando este trabajo en esta misma legislatura

en consideración ya lo hemos hecho en la votación de esta proposición de ley un trabajo

hicimos un trabajo importante porque se modificó de una manera sustancial

y aún se puede mejorar ese es nuestro propósito aún se puede mejorar en el trámite

que van a acompañar toda esta elaboración de esta futura ley que

las enmiendas el trabajo en ponencia o sea que en ese sentido estamos abiertos a esa mejora de una ley que es necesaria nosotros también

en el trabajo en la anterior legislatura desde luego con muchas enmiendas con muchas aportaciones que también modificaron algunas de las cuestiones que trataba el proyecto de ley inicial

deportiva la presencia del deporte en el país vasco su red federativa sus importantes clubes en distintos deportes las especialidades autóctonas la importancia de la iniciativa privada vinculada a la actividad física hacen que en el siglo veintiuno ya bien entrado el siglo veintiuno

a la organización a la formación deportiva como ya lo están haciendo muchos países muchas comunidades autónomas de nuestro entorno sin ir más lejos

racional de esta profesión deportiva de estas profesiones deportivas

tuvimos en consideración en la ponencia anterior la identificación del periodo transitorio de aplicación de la ley

de grandes profesionales del deporte que llevan ejerciendo

sin la titulación que la ley requerirá y yo creo que también tiene que servir un paso como este y

para realizar desde el parlamento un reconocimiento a esas personas que sin ser profesionales han sido

de entidades deportivas y que han estimulado desde luego a la juventud y al país en la práctica deportiva yo creo que esto también tiene que ir en relación con eso por eso también será importante esa cuestión de homologación de que tanta gente

la fuerza de las cosas ha tenido que ejercer esas profesiones y que será necesario desde luego tenerlas en cuenta nosotros para finalizar hubiesemos preferido no una proposición de ley hubiesemos preferido un proyecto de ley es decir en

como un proyecto ley yo creo que es bueno que venga como un proyecto ley fue un proyecto ley modificado sustancialmente en el trámite de ponencia por el debate de enmiendas y por la articulación de algunas transacciones y de algunos acuerdos

lo regulado en el proyecto de ley inicial y hubiese sido bueno haber traído un proyecto de ley y digo por qué un proyecto de ley tiene en primer lugar un dictamen jurídico de la cojua en relación con algunas de las cuestiones que hemos hablado y un proyecto ley tiene otros dictámenes otros informes

en una ley tan importante como esta que aborda una casuística

las alegaciones de los colectivos afectados eso es un elemento fundamental nos hubiese gustado haber analizado desde luego en un proyecto ley no en una proposición de ley que no lleva aparejado

académicos que federaciones que clubes que disciplinas excluidas o posiblemente excluidas de este proyecto ley que otras profesiones concurrentes

lamentablemente no ha sido así pero en cualquier caso participaremos activamente en la elaboración

desde elkarrekin podemos nos hemos abstenido porque a pesar de ser una ley trabajada en la legislatura pasada

en concreto en el ámbito de la igualdad que como todos saben en el mundo del deporte es especialmente alarmante las desigualdades que se dan

en el ámbito de la actividad física del deporte todavía queda mucho trabajo por hacer sobre todo en la práctica federada y profesional personal técnico personal directivo

según un informe de este departamento solo el veinticinco por ciento de las profesionales que ocupan estos puestos de trabajo son mujeres

como ya se ha dicho anteriormente el deporte y la actividad física en sus múltiples variantes cada vez está más presente en nuestra sociedad

y este cada vez es más variado de los tradicionales fútbol baloncesto o balonmano

y desde nuestro grupo parlamentario opinamos que esta ley es importante y es necesaria en euskadi hay cuatro mil seiscientos instalaciones deportivas y veinte mil profesionales

a que se regule su profesión a que se aclare cuáles son sus ámbitos de actuación esta ley tiene un gran impacto en el mercado laboral y empresarial pues lo variado de las profesiones que conviven en el sector de la actividad física y el deporte

diferentes niveles de cualificación hace que se produzcan encontronazos desde los diversos colectivos

y esta es la principal causa de queja y de malestar dentro del sector

esta iniciativa está encima de la mesa desde el dos mil once

superando el período de ponencias y de enmiendas llegando a su recta final donde no pudo ser completada

desde nuestro grupo parlamentario esperamos que con el trabajo ya avanzado y en poco tiempo se pueda aprobar esta ley con el máximo consenso posible